egun on guztioi bueno si me permiten

asistiendo a un debate para mí desolador estamos escenificando una situación

en la que no hay nada absolutamente nada que se haya hecho bien y en el que el único culpable

de lo que está pasando en este país es el gobierno y si quieren el pnv de hecho señor matute usted

no hay nada más no hay un problema de pensiones en este país no hay un problema de mujeres viudas no hay un problema de prestaciones de desempleo

no hay nada este gobierno en palabras del lehendakari

la responsabilidad de gobierno ha afirmado que iba a trasladar a la sociedad

y eso ha hecho y eso está haciendo y eso va a seguir haciendo mire señor matute

ha dejado de pagar la deuda de pagar el cupo o es que no le lastra la deuda también a la diputación de gipuzkoa los ingresos que tiene cada institución no se han acordado de común acuerdo

en el seno del consejo vasco de finanzas son mensajes que hay que trasladar de la manera más objetiva posible a la sociedad en este país de común acuerdo hemos decidido cuales son los ingresos de cada administración y evidentemente

no vale utilizar datos de evolución del empleo cuando van mal y no dejar utilizarlos cuando no van quizá tan mal yo nunca he dicho señora mendia que haya mil doscientos ochenta y cinco parados

nunca he dicho eso yo dije textualmente porque mido intento medir mis palabras que son datos más positivos que son datos más positivos y los son

del paro registrado comparado con octubre del año pasado

señora garrido que el paro evoluciona peor en euskadi que en españa en octubre un cero coma setenta y seis de crecimiento en euskadi un uno coma dieciocho en españa de las altas en seguridad social diez mil altas en seguridad social en euskadi el dato más positivo de los últimos diez años

que también sería bueno valorar entre todos y entre todas se ha hablado de la educación el fracaso escolar la tasa de fracaso escolar en nuestro territorio es del siete coma siete por ciento del doce coma ocho por ciento en europa

y no palabras gruesas que se transforman en palabras huecas el cuarenta y tres por ciento de nuestros jóvenes son titulados universitarios el veinticuatro por ciento en europa la tasa de riesgo

un veintisiete por ciento en españa un veinticuatro por ciento en europa

está bien señora mendia y lo oímos con agrado

para un acuerdo presupuestario y en ese sentido estamos deseando conocer cuáles son sus aportaciones para ver si podemos llegar

no se nos diga que de tanto ensalzar el sistema olvidamos a los que no llegan ensalcemos juntos el sistema señora mendia

entre todos no es patrimonio de nadie lo ha dicho la señora arregi en su intervención

hace veinticinco años recuperemos ese consenso es responsabilidad de todos y de todas pero hagamos frente a la situación cuando el ataque también viene

se reclama el liderazgo en políticas a los más desfavorecidos señora garrido

y lo hace usted paradójico cuando menos y se dice que la pobreza crece más rápido en euskadi utilizando

un indicador del informe foessa que tiene su explicación y no utilizando el resto del conjunto de indicadores

por qué ese énfasis por qué esa intención en trasladar que en euskadi

qué interés tienen ustedes en ello no sigan diciendo lo que no es no ha habido ningún en ayudas a la conciliación ninguno ha habido un atraso o está existiendo un atraso en el pago en el mes de enero se pagarán

de conciliación que se han suscitado en los meses hasta el mes de diciembre todas y cada una de ellas y el decreto seguirá en vigor

lo que no es no se trate de engañar a la sociedad critíquesenos sin duda critíquesenos por aquello que hacemos mal critíquesenos por haber tardado por haber retrasado los pagos sabiendo que eso tiene incidencia en las familias pero no se diga lo que no es siete años llevamos de crisis y seguimos aguantando

no nos comparamos con españa señor matute nos comparamos con europa y con países

incluso con sociedades europeas de las más avanzadas y creo que eso es positivo para todos y no es logro exclusivo de este gobierno es logro de la sociedad vasca en su conjunto

se dice también de manera diría que torticera por parte de unos y de otros que el gobierno

mendia yo sin embargo creo que el gobierno

claramente de frente para defender el sistema de protección social para defender a esas sesenta y cinco mil personas a las que se está poniendo en cuestión

no hemos hecho de notarios sino lo que hemos hecho es mejorar día a día la gestión de lanbide

así reconocido señora mendia con todas esas asociaciones con las que me alegro que se haya juntado porque yo lo hago habitualmente todas ellas reconocen que lanbide funciona mejor imagino que así también se lo habrán trasladado por eso no se ha puesto de perfil

en marzo un plan de choque por el empleo y por la reactivación económica mejor o peor criticable o no pero un plan de choque de frente

y no engañando a la sociedad y por fin señor matute y para todos los demás no insistan en mi futuro en esta cámara como consejero de empleo y políticas sociales y lo haré hasta

con absoluta responsabilidad no tengan de eso ninguna duda critíquenme por lo que hago en este gobierno y no por ninguna otra cosa osoko

nabarmentzen da eta non gauden jakin nahi genuen aportaré primero datos sobre la evolución y situación actual del empleo haré un pequeño balance de cuál es el resultado del programa marco de empleo

y finalmente resumiré el estudio sobre pobreza y desigualdades sociales estudio que ya hemos puesto a disposición en cada uno de los grupos parlamentarios

está colgado en la página web de nuestro departamento sí señor maneiro lo acabamos de poner en manos de los grupos no me diga que no

las oficinas de lanbide registraron ciento setenta mil ochocientos veintidós personas en desempleo

más en relación a septiembre un cero coma setenta y seis por ciento superior los datos interanuales son sin embargo

más positivos del paro registrado en el mes de octubre del año pasado nos sitúan con cerca de siete mil personas menos registradas

un descenso de más del cuatro por ciento por eso hablamos de tendencias porque creemos que estar todos y cada uno de los meses con cifras

y también a un análisis que tiene que ver mucho con lo estacional sabiendo sabiendo que lo dramático es la situación de todas y cada una

por su parte para final de año se prevé una tasa de paro del quince coma tres por ciento y del

en términos de encuesta de población activa actualmente estamos en

de este año hasta el momento actual en cuanto a la afiliación a la seguridad social

el año el mercado laboral vasco va dando síntomas de recuperación los últimos datos de lanbide referidos a la seguridad social ratifican esta impresión puesto que en octubre la afiliación volvió a subir en diez mil quinientos ochenta y ocho personas tras un septiembre que también cerró en positivo

en cuanto a las contrataciones durante el mes de octubre el número de contrataciones en nuestra comunidad fue de ochenta y tres mil quinientos seis de las cuales cinco mil quinientos setenta y seis

fueron de carácter indefinido el número total de contratos fue un ocho coma nueve por ciento superior al de octubre de dos mil trece

al de septiembre de dos mil catorce realmente creo que aquí tenemos de las bases del problema y es que el empleo que se está generando es un empleo precario es un empleo temporal y las consecuencias también de la reforma laboral están afectando a las condiciones

sobre un empleo débil no es posible construir una sociedad fuerte

en la medida de sus posibilidades con todos y cada uno de los planes que se han ido citando durante el mes de octubre

el crecimiento del pib en el tercer trimestre de dos mil catorce ha sido del uno coma tres por ciento interanual cuatro décimas más que el trimestre anterior

gracias a una recuperación seguramente de la confianza la composición del crecimiento en euskadi conoció un cambio respecto al modelo seguido en los trimestres anteriores en el sentido de que el saldo exterior dejó de aportar décimas al pib e incluso

mientras que todo el impulso provino de la demanda interna en concreto la demanda interna aumentó un uno por ciento interanual mostrando una fortaleza desconocida en los últimos seis años los datos macroeconómicos y las expectativas de crecimiento y empleo están mejorando

y la previsión para el que viene es del uno coma siete por ciento limitado pero crecimiento

según esta fuente la recuperación mundial se mantiene a una intensidad moderada sin embargo las perspectivas son desiguales para las diferentes economías

también se ven algunos nubarrones las previsiones económicas que ha hecho públicas el pasado martes la comisión europea respecto a españa y a toda la zona euro plantean

los cálculos de la comisión para el reino de españa se quedan por debajo de las previsiones realizadas desde madrid así el informe de otoño publicado esta misma semana

y un uno coma siete para el dos mil quince cuando las cuentas del gobierno de rajoy

por un dos por ciento para el dos mil quince según la comisión

no bajará del veintidós por ciento hasta por lo menos dos mil diecisiete euskadi está ya hoy por debajo del quince por ciento no es autocomplacencia

por ese quince por ciento además la comisión europea cree que españa no cumplirá con el objetivo de déficit de este año ni el siguiente el objetivo de este gobierno sí es cumplir con ese déficit

en lo que va de año el seguimiento de las acciones en ejecución nos arroja algunos datos que les voy a aportar casi la totalidad de las acciones previstas están ya en ejecución noventa y seis por ciento la previsión del impacto se mantiene en los siguientes términos

fundamentalmente en pymes y ciento diecinueve mil trescientos cincuenta y uno personas apoyadas en el aumento de su empleabilidad

objetivos son datos reales son datos seguramente no suficientes pero pensemos también en cuál sería el coste real

han formulado este gobierno no hubiera hecho nada me imagino que también les importan las personas detrás de estos datos a continuación voy a presentar algunos datos del módulo de pobreza y desigualdades sociales que se extraen de la encuesta que con dos años de antelación ha realizado el órgano estadístico específico del departamento de empleo y políticas sociales

no teníamos obligación de hacerla la hemos hecho porque queríamos ver cómo evolucionaba la situación en estos dos años y no la hemos tenido hasta estos días señor matute

en el pleno del viernes pasado les di unos datos que eran los únicos que teníamos en ese momento y hemos estado día a día

pregunte en el departamento tiene forma de hacerlo y no tenga duda de que es así a diferencia de otras crisis del pasado además el aumento asociado del desempleo ha afectado a personas mayores

muchas de ellas con responsabilidades familiares la mayor expresión de esta realidad es que más del setenta y cinco por ciento de las personas que sufren hoy en nuestro país situaciones reales de pobreza se vinculan a parejas con hijos e hijas y a familias monoparentales entre dos mil ocho y dos mil catorce

trece coma cuatro por ciento de sus ingresos corrientes una proporción que todavía es del ocho coma dos por ciento en el siguiente tramo del diez al veinte por ciento

entre el veinte y el treinta por ciento solo el cincuenta por ciento más favorecido de nuestra sociedad dispone en dos mil catorce de ingresos superiores

en términos corrientes entre dos mil doce y dos mil catorce siguen aumentando los factores que presionan al alza el impacto de las situaciones de pobreza y de precariedad la crisis sigue afectando entre estos factores tenemos en primer lugar la insuficiencia de ingresos repuntan además al alza la pobreza y la precariedad relacionadas

con la insuficiencia coyuntural de ingresos sino la que tiene que ver con las condiciones de vida

es decir con la pobreza o con la ausencia de bienestar de acumulación y con la posibilidad o no

en su conjunto las distintas formas de ausencia de bienestar en la dimensión de acumulación afectan en dos mil doce a un veinte por ciento de la población

por debajo del veinticinco coma tres por ciento de mil novecientos noventa y seis y crece dos punto cinco puntos frente a dos mil doce concretando

del cuatro coma dos por ciento de la población al cinco coma nueve por ciento y la ausencia de bienestar del cuatro por ciento al cinco coma seis por ciento estos porcentajes pasados a personas dicen que hay

a esto hay que sumar que en situaciones de ausencia de bienestar están

en dos mil catorce agrupando estaríamos hablando de alrededor

que padecen de alguna forma la ausencia de bienestar en euskadi es poco el tiempo que tengo pero creo que sería muy importante ser capaces de trasladar qué hay detrás de cada uno de estos conceptos cuando hablamos de pobreza real de ausencia de bienestar

etcétera desde dos mil doce en términos relativos las personas que padecen otra forma de ausencia de bienestar se han incrementado más que las que padecen directamente la pobreza real en cuanto al impacto sectorial y territorial de la pobreza y la precariedad destaca el deterioro de la situación en álava

tanto de la pobreza como de la ausencia de bienestar real sin pobreza por territorios entre dos mil doce y dos mil catorce hay que resaltar el impacto diferencial del aumento de la pobreza a los territorios de álava y gipuzkoa

por un menor impacto de los problemas de pobreza y precariedad

en gipuzkoa donde menos partiendo de una tasa además más baja y partiendo de una tasa de pobreza más elevada

de los problemas en el período de crisis el sistema de de pcv y de ayudas de emergencia social sigue tendiendo un impacto positivo

más graves de la pobreza contribuyendo a mantener en niveles bajos los indicadores de percepción subjetiva de presencia del fenómeno de la pobreza euskadi es hoy más pobre y más desigual que lo era en dos mil ocho esa es una realidad lo es sin duda

lo es mucho menos de lo que sería si nuestra sociedad no hubiese apostado por mantener su sistema de garantía de ingresos centrado ante todo

defendiendo el sistema sino que la realidad es que el sistema defiende sobre todo a las personas más vulnerables y esa debe ser nuestra apuesta gracias a esa apuesta

seguimos contando con un modelo social competitivo en europa porque es preciso decir que sin ese sistema de protección social

que había perdido el trece coma cuatro por ciento de sus ingresos habría perdido un veinticinco coma siete por ciento

perdido el ocho coma dos por ciento lo hubieran hecho en un trece coma cinco por ciento

en un ocho coma siete por ciento la rgi ha reducido el impacto de la crisis

de las personas que peor lo pasan en nuestra sociedad este dato por sí solo debiera ser suficiente para ser capaces de unirnos juntos de unirnos todos y poner en valor nuestro sistema la rgi cubre en euskadi las carencias que deja abiertas el sistema

casi un cuarenta y dos por ciento de los ingresos totales de las personas detectadas por la pobreza en euskadi

por un veintitrés coma dos por ciento del sistema general de protección del estado una sociedad exhausta una sociedad exhausta que no ve cómo sus transferencias a familiares amigos y vecinos muchas de ellas seguramente

disminuye en los últimos años solo contribuye con un seis coma nueve por ciento a los ingresos de estas familias las transferencias entre familiares

no les quepa la más mínima duda este esfuerzo de solidaridad tiene un claro reflejo social lo podemos ver al compararnos con la situación española

por debajo del cuarenta por ciento de la mediana de ingresos en españa en dos mil trece la proporción es del tres por ciento en euskadi en términos del umbral español

o pagos atrasados la proporción es del seis coma dos por ciento en euskadi

en hogares que no tienen capacidad para abordar un gasto extraordinario en españa la proporción es del veintidós coma cinco por ciento en euskadi

superior al veinticinco por ciento en españa euskadi se mantiene por debajo del quince por ciento

como decía antes no solo puede compararse con españa sino con algunos países punteros de europa

alemania comparemos algunos datos que ha hecho posible nuestra política social

sí pero un cinco coma cuatro por ciento en alemania un tres coma uno por ciento de personas con dificultades para acceder a una comida proteínica cada dos días pero un ocho coma cuatro por ciento en alemania un veintidós coma cinco por ciento de personas que no tienen capacidad para hacer

treinta y dos coma nueve por ciento en alemania es verdad que euskadi ha atraído en los últimos años a personas en situación de necesidad

tanto españolas como extranjeras pero lo que ha atraído a estas personas ha sido la percepción de que euskadi aún era una tierra de oportunidad una tierra de trabajo que era lo que venía siendo hasta el año dos mil ocho españa mientras la inmigración huía de españa desde finales de la pasada década hasta dos mil doce al menos seguía acercándose a euskadi porque seguíamos siendo

y laboralmente digámoslo claro es evidente que podemos mejorar nuestro sistema de protección es evidente que seguimos siendo la referencia también de otros que lo han dejado de ser y es evidente

pero si a algo ha contribuido nuestro sistema de garantía de ingresos

a que aún hoy nos podamos ver como una tierra de oportunidad y ese futuro de oportunidades al que ha contribuido nuestro sistema de protección es a lo que no estamos dispuestos

en la población extranjera forzando la salida de euskadi de esta población algo que de partida no podríamos aceptar desde meros principios y de solidaridad pero hay algo más una sociedad como la vasca no puede permitirse el lujo de renunciar a integrar a todos aquellos que viven en ella necesita de todas sus fuerzas para hacer frente al reto del mantenimiento de un estado de bienestar que en las próximas décadas

de nuestra población una población a la que habrá que pagar las pensiones

y facilitar los cuidados y servicios sociales que necesitan la correcta integración de la población inmigrante es así una condición también de nuestra propia supervivencia como sociedad y por eso cuando se ha dicho esta mañana que se me llena la boca o que saco un conejo de la chistera

quiero decir claramente que no lean tanto los periódicos que se ciñan a lo que yo dije

que mirando al futuro no al año que viene mirando al futuro o nos preocupamos del envejecimiento de la población con la influencia que va a tener en las tasas de dependencia y para ello afrontamos el problema o porque no afrontemos el problema

que las sigo manteniendo son propuestas mías no de nadie más y que son propuestas que personalmente vengo haciendo desde el año dos mil cuatro como se podrá comparar si se leen los archivos de las juntas generales de bizkaia no hay mayor expresión de la crudeza de la crisis actual

que la evolución de los ingresos de la parte más desfavorecida de la sociedad he dicho lo que ha perdido las capas de población que están en el treinta por ciento más bajo

llegarían a más de un veinticinco por ciento de pérdida en las más bajas la realidad sin embargo es que el efecto de la crisis habría sido por tanto

mucho más profundo en las personas más vulnerables pero no todo no todo lo puede resolver

el futuro de euskadi depende ante todo de la consolidación de un sistema productivo competitivo en el contexto de la globalización y de un buen sistema de pensiones

que puede tener la población en recurrir a nuestro sistema de ayudas sociales debiéramos ser

la última red que cuando todo lo demás ha fallado acudimos

para atender a más población no es posible obviar el hecho de que se trata de una vía efectivamente de último recurso por eso es preciso reflexionar sobre las razones por las que más de sesenta y cinco mil unidades familiares en euskadi necesitan acceder

detrás de ello están sobre todo las limitaciones de un sistema general de protección del estado

demasiado bajas y en prestaciones de desempleo de duración cada vez más limitada y de menor cuantía las mujeres viudas son despreciadas

requiere ampliar la reflexión al conjunto del sistema económico a la reforma laboral que ha precarizado las condiciones de trabajo al salario mínimo interprofesional que es prácticamente la mitad del de francia del de irlanda del de bélgica del de holanda

euros de luxemburgo es cierto en todo caso que la crisis económica está colocando a europa y de forma especial a los países del sur en una posición delicada con muchas incertidumbres sobre el futuro que está por venir

parece venir acompañada de una pérdida de perspectivas de futuro para nuestras propias clases medias el reto mayor al que se enfrenta euskadi es seguir consolidando seguir consolidando un modelo social que sea capaz de ofrecer perspectivas de futuro para toda la población de nuestro país

debe ser seguramente repensado en algunos aspectos entre todos y del acierto de las respuestas dependerá sin duda el bienestar futuro de la sociedad vasca termino con aportarles algunos datos comparativos de las diferencias que existen entre el informe foessa y la encuesta de pobreza y desigualdades sociales la muestra del informe foessa en hogares es de seiscientos cincuenta y seis la nuestra de cuatro mil cuatrocientos veintidós y en rgi en nuestro caso

quinientos veintinueve personas en total la muestra de población es siete veces prácticamente un seis coma siete por ciento exactamente en nuestra encuesta que en la del

recoge una muestra específica de titulares de rgi pero algunos datos comparativos en el informe foessa la exclusión severa llega al cinco coma dos por ciento en nuestro caso la pobreza real

del informe foessa la integración precaria al cuarenta y cinco coma tres por ciento en nuestro caso el bienestar no completo

la integración llega al ochenta y tres coma cuatro por ciento y en el caso de la nuestra el bienestar al ochenta y ocho coma cinco por ciento son datos por tanto que

y es cierto pero no desolador ni por nuestras intervenciones ni por las suyas sino por la crudeza de los datos

y usted siga comparándonos con alemania haremos un vente a alemania pepe que decía aquella película comparémonos con lo que éramos y con lo que teníamos hace dos años y quizás así nuestros ciudadanos y ciudadanas van a entender mejor eso yo le voy a decir una cuestión previa

porque he podido trabajar con ellos en más de una ocasión yo no insisto en su futuro no he insistido en su futuro en una clave personal porque yo a las personas las respeto en todo caso lo que combato las ideas y lo que he hecho ha sido combatir sus ideas

al departamento en la medida que usted se va a mitad de legislatura esa es una realidad objetiva y yo no la he criticado yo no la cuestiono simplemente digo que esa realidad objetiva puede afectar

del departamento ante una materia que parece tan importante y le creo para usted también como es esta únicamente he señalado eso

actúa más de notario que ir de frente somos torticeros

antes le voy a decir una cuestión yo le he escuchado con suma atención probablemente usted no

que no hemos hablado de las pensiones lo he hecho en la página seis de manera reiterada

nos dice que no hemos hablado de las mujeres viudas y lo hemos hecho en la página dos no era tan difícil desconectar el discurso porque apenas llevaba tiempo porque hablo bastante deprisa

y lo hemos hecho en diferentes páginas probablemente lo que ha habido es una falta de escucha

los servicios de la cámara y nos dice que le miramos todo el rato al gobierno y es normal pero no lo tome como una afrenta

porque usted sí puede decirnos que está haciendo y que no está haciendo nada más que por eso qué voy a mirar al señor de upyd para pedirle responsabilidades teniendo en cuenta su dimensión política y social en este país y las responsabilidades de gobierno que tiene

lo que no entiendo es que nosotros nos creamos más sus capacidades que ustedes mismos porque parece que despejan la pelota yo le saludo directamente claro y les interpelo directamente claro como usted lo hace con gipuzkoa por cierto hacía nosotros pero no se evada no huya de las responsabilidades que a buen seguro sabe que tiene

nos habla luego de gipuzkoa no podía faltar no podía faltar gipuzkoa luego le voy a hacer mención a eso en relación con este informe

cuando ya habían intervenido todos los grupos de la oposición un informe que habla sobre las necesidades sociales en un pleno que se daba hoy que era sobre pobreza

que pedía una estrategia integral contra el paro y la pobreza por tanto no ha habido

pero como decía conociéndose de antemano con mucha antelación este debate conociendo como conocíamos que existía ya una encuesta y que la encuesta ya estaba terminada este parlamento se ha tenido que enterar hoy a las once once cuando todos los grupos de la oposición ya habían hablado

una artimaña de muy mal juego parlamentario porque si nosotros hubiéramos podido disponer de estas datos como usted lo ha hecho con cierta antelación quizás podríamos ver

el del todo cierto o no yo me voy a referir solo a uno no me ha dado tiempo a mirar más

que se dicen cosas como que siguen agravándose entre dos mil doce y dos mil catorce los factores que presionan al alza el impacto de las situaciones reales de pobreza y precariedad

sobre la situación de pobreza o en este caso de falta de bienestar para ser más exacto

pues vamos a ver la encuesta lo que dice por diferentes herrialdes y vamos a ver que usted ha hecho una lectura entiendo que interesada

interesada de los datos porque nos ha señalado que en álava y en gipuzkoa

las cosas no se están haciendo del todo bien mientras que en bizkaia que la cosa está un poco mal se está haciendo un poco mejor pues voy a leer literal sin interpretación como usted ha hecho un párrafo el tercero de la página diez

tienen el mismo sentido en lo relativo a la tasa de ausencia de bienestar real que es de lo que habla este apartado esta aumenta en álava del seis coma cinco en dos mil ocho a nueve coma siete en dos mil doce y quince coma tres en bi mila hamalau eso dice sobre álava

el incremento es también una realidad pero resulta más moderado pasando del diez coma uno por ciento en dos mil ocho a once coma tres en dos mil doce y doce coma ocho en dos mil catorce doce coma ocho en dos mil catorce en bizkaia

después de aumentar de forma significativa en gipuzkoa entre dos mil ocho y dos mil doce de cinco coma siete a ocho coma dos quién gobernaba de dos mil ocho a dos mil doce mayoritariamente en ese tiempo creo que ustedes la tasa se reduce al siete coma siete en dos mil catorce

el resultado es que como sucedía con la pobreza la tasa más elevada de ausencia de bienestar vuelve a corresponder a álava eso es lo que dice la literalidad de esto que nos ha

de muy mal gusto que puede caracterizar también a quien la ejerce nos dice como decía que señalamos que

porque señalamos que el gobierno se pone como un notario peroes que la calle hoy está diciendo

de los datos nos habla de los datos de desempleo nos habla de la renta de garantía de ingresos nos habla de las políticas sociales no nos habla de cuál es la situación industrial de este país y cómo hemos perdido tejido industrial y cómo hemos perdido empleos de manera sistemática y cómo la consejera de gobierno que está a su lado ha venido a este pleno reiteradamente a decir que

eso es ponerse de perfil eso es lo que se ha hecho y se ha hecho con fagor se hace con los trabajadores de candy y se hace con todo el mundo y eso es dramático a usted

y creo que es legítimo que lo expresemos así lo que no entiendo es que eso pueda molestar

pero es que resulta que lo que hay que hacer es comparar con el dos mil doce aquí es mucho más fácil cómo vivíamos nosotros cada uno de nosotros y nosotras en el dos mil doce y la gente que nos rodea y la gente que tenemos a nuestro alrededor y cómo vive ahora y la se reduce en una foto peor claro pero es que en ese tiempo ustedes han gobernado y parece que se contentan con decir es que si no lo hubiéramos hecho nosotros estaríamos todavía mucho peor

porque era una noticia de actualidad que le gusta el fútbol comparto esa afición con usted

viene a ser algo así como el de un entrenador que le fichan para que su equipo no baje división y nos dice no no

parece que es lo que nos ha dicho nos decía la representante del partido nacionalista vasco o nos recordaba las ciento cincuenta propuestas yo hoy las he sintetizado en cuatro acuerdos y lo vuelvo a decir nosotros planteamos cuatro acuerdos

que haya un plan de empleo claro que actúe sobre la economía real y que deje de lado la especulativa y el cemento he hablado de una reforma profunda fiscal equidistributiva

y he hablado de dotarnos de herramientas propias de soberanía para poder hacer frente a todo aquello que ahora décimos que nos gustaría hacer y no podemos porque no tenemos soberanía todo eso recoge en buena medida estas ciento cincuenta propuestas que no las saco hoy aquí para dárselo a los grupos que cuando lo publicamos se lo entregamos a casi todo el mundo que lo quiso por lo tanto si usted lo ve y lo verá en las propuestas de resolución no hemos dejado nada de lado lo hemos sintetizado para intentar

vamos a los contenidos porque no vale cualquier acuerdo valdrá un acuerdo que garantice y dignifique la condición de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas que garantice los puestos de trabajo y que garantice que nadie en este país

de forma indecente esa es la realidad y nos dice que el empleo no se crea por decreto y yo en eso estoy de acuerdo con usted

que el empleo no se cree por decreto lo que sí que vemos es que se destruye por decreto

por cierto como el partido popular al que tanto critican y nos ha hablado de lehen aukera del plan de empleo

lo bien que le parece a alguna gente se le ha olvidado decir si acaso y no parece baladí ni parece un objeto menor que la egk el consejo de la juventud de euskadi no hace la misma valoración que usted ha hecho aquí

ni es aukera que lo único que plantea son contratos de prácticas de quinientos euros por ocho horas de jornada laboral porque ese es el modelo al que empujan a la juventud bueno déjeme terminar luego tienen réplica

ustedes se empeñan en seguir por el mismo camino y si siguen por el mismo camino nos encontraremos con los mismos resultados y los resultados son los que son y en el dos mil doce

este debate no será desolador será desgraciadamente catastrófico esa es la realidad por tanto

en profundidad sobre cosas concretas lo que nos gustaría es que se pudiera hablar de todo eso con mucha más
hondura de lo que se ha hecho hoy aquí besterik ez mila esker eskerrik asko

sí muchas gracias presidenta señor consejero al señor matute se le ha entregado la encuesta de necesidades sociales dos mil catorce a las once once

señalándome que un asistente del grupo nacionalistas vascos había pasado por nuestro grupo para hacérnoslo llegar y esto a mí me parece absolutamente bochornoso y vergonzoso ni siquiera es el propio gobierno el que entrega a los grupos esta encuesta

el que va grupo por grupo en pleno debate monográfico cuando todos los portavoces hemos intervenido haciéndonos la entrega de esa documentación que supongo que el grupo nacionalistas vascos

en fin yo creo que ustedes contaban con que no pudiéramos haber tenido acceso a los datos que usted nos ha

tenemos datos sobrados que confirman todas las cosas que hemos venido diciendo

por prácticamente la totalidad de los grupos parlamentarios porque quizás usted no contaba con que ya desde ayer

con los datos aportados por la fundación foessa y yo creo que estos datos perfectamente conocidos

su discurso datos tenemos y no hemos mentido son los datos reales que incluso usted mismo resumiendo esta encuesta a confirmar y los datos son extraordinariamente preocupantes porque no se crea empleo y desde luego no se crea empleo estable y de calidad y la pobreza sigue incrementándose en euskadi esta es la realidad y es su responsabilidad

decía que hemos asistido a un debate desolador donde el único responsable es el gobierno vasco y el partido nacionalista vasco nosotros no hemos dicho eso hemos apuntado a las políticas económicas que se han impulsado desde europa a las políticas económicas y a determinadas decisiones gravísimas impulsadas por el gobierno de españa

a las medidas también impulsadas y a las medidas que no ha querido impulsar este mismo gobierno el gobierno vasco ayer se me dijo desde los escaños del grupo nacionalistas vascos que mire más a euskadi lo mismo les digo yo a ustedes

que miren los datos en euskadi que dejen de compararse insistentemente con el país que peor está de europa que es lo que reiteradamente hacen sino que comparen los datos existentes en euskadi y la evolución de los mismos desde los últimos años

y problemas muy graves que el desempleo se incrementa o al menos no se reduce que el empleo que se crea es precario e indigno y que la pobreza

la realidad según usted no hay pobreza ni paro ni problemas sociales ni ciudadanos que lo están pasando mal o mejor dicho efectivamente sí existen estos problemas porque usted los ha apuntado basta con ver

pero usted lo que pretende es que los grupos de la oposición no se lo recordemos

porque los grupos de la oposición lo que hemos hecho es recordarle a usted y a su gobierno cuáles son los datos ciertos esto es lo que hemos hecho

pero viene a pedirnos a los grupos de la oposición que por favor no se lo recordemos pues sí

tenemos que recordar y usted además ha reconocido que el empleo es precario y de baja calidad y culpa de ello que no sin razón al gobierno de españa por lo tanto

muchos políticas económicas que se han aplicado en europa políticas económicas y decisiones desastrosas aplicadas por el gobierno de españa pero en fin también las medidas que ha impulsado o los recortes sociales que ha habilitado este gobierno vasco cómo no se lo vamos a decir cuáles son los resultados señor consejero de las políticas que han venido aplicando durante los últimos dos años del plan de empleo

cuáles son los resultados se sienten ustedes orgullosos de estos resultados

no tienen ustedes ninguna responsabilidad no pueden hacer nada más para dar la vuelta a esta situación no pueden hacer nada más nosotros pensamos que sí nosotros pensamos que pueden hacer mucho más por ejemplo

empezar a cumplir algunos mandatos parlamentarios de esta cámara

sin ir más lejos en base a las competencias de las que dispone este gobierno dejémonos

por este momento de acordarnos de las decisiones tomadas por el gobierno de españa pensemos en las decisiones que puede tomar este gobierno estamos en el parlamento vasco miremos a euskadi están ustedes obsesionados con la situación de españa e insisten permanentemente que en el resto de españa eso ya lo sabemos pero pensemos y piensen ustedes qué es lo que podemos hacer señor consejero va a presentar el gobierno vasco

hace un año este parlamento un plan contra la pobreza va a presentar un plan contra la pobreza infantil va a poner en marcha este gobierno medidas concretas y específicas para luchar contra la pobreza energética

los distintos acuerdos parlamentarios en relación a las ayudas de emergencia social va a cumplir esos mandatos parlamentarios porque esto depende de su gobierno

o va a impulsar y seguir impulsando nuevos recortes sociales contra la ciudadanía va a defender y a fortalecer el estado

se compromete a perfeccionar pero para fortalecer el sistema vasco de protección social se compromete específicamente a ello luego lo veremos en las diferentes propuestas de resolución que nosotros vamos plantear se plantean alguna idea novedosa

alguna medida nueva en relación a lo que ya se ha hecho durante estos dos años y que se ha demostrado que es absolutamente insuficiente para salir de la situación o van a seguir reiterándonos durante los próximos meses los planes que ya han puesto en marcha y que no han servido para dar la vuelta a la situación va a quedarse el gobierno quieto parado u observando los hechos y la realidad va a plantear alguna medida novedosa va a impulsar este gobierno

del entramado institucional vasco va a plantear la modificación de la ley de territorios históricos para acabar con las duplicidades y las ineficiencias existentes

societario o todo eso está ya olvidado y no se va a llevar acabo en los próximos meses no van a plantear ninguna medida novedosa para crear estable digno y de calidad tampoco en esto en fin la situación es muy grave las medidas que ustedes han tomado

prácticamente para nada por lo tanto la exigencia de los grupos de la oposición y desde luego de upyd es volver a poner encima de la mesa nuevas medidas y recordarle al gobierno que efectivamente no está solucionando ninguno

también queremos denunciar la actitud de este gobierno con absoluta premeditación y alevosía

y no ha sido además el propio gobierno el que ha remitido este informe a los grupos como digo un informe esencial imprescindible para hoy hacer un buen debate señor consejero

o bien un buen debate o un debate real sobre la situación de euskadi en relación al desempleo a la pobreza y a las personas en situación de exclusión

los datos de este informe me parece que no ha sido jugar limpio señor consejero no está el señor lehendakari se lo digo a usted y a los consejeros que están aquí presentes miembros de este gobierno

que aparecen en esta encuesta de necesidades sociales de dos mil catorce el pasado pleno de control del viernes pasado usted por lo tanto creo que no ha dado toda la información de la que disponía una información muy necesaria para hacer un debate de verdad a la altura de la situación señor consejero mire y en cuanto a las referencias

en relación a la legitimación del sistema de protección le voy a decir lo siguiente precisamente legitimar

de protección social de prestaciones sociales que tenemos que por cierto es uno de los más avanzados

sino de europa y muy destacable también

que van a ser más en los próximos presupuestos creo que unos cuatrocientos sesenta millónes de euros

es poner en evidencia las cosas que no funcionan del sistema y deslegitimar el sistema que es lo que está haciendo este gobierno y usted como responsable del departamento de política y asuntos sociales que ya siento que esto le moleste últimamente

es no querer mirar la realidad es no querer reconocer la realidad

este gobierno mirar para otro lado eso es deslegitimar el sistema y eso es no hacer nada precisamente por garantizar la sostenibilidad y habilidad

me hablaba de las ayudas a la conciliación esa es una prueba clara y ya siento que les moleste y además con iniciativas concretas e impulsadas por este grupo y por otros grupos con representación en esta cámara digo que el tema de las ayudas a la conciliación y el recorte en las ayudas a la conciliación

una disminución ya de la partida presupuestada para satisfacer las demandas y la solicitudes en relación a las ayudas a la conciliación

digo que el recorte y la decisión de no ampliar la partida presupuestaria y cerrar el grifo a las ayudas a la conciliación es un claro ejemplo del retroceso en la política social de este gobierno y para este grupo

es una absoluta prioridad y por eso le planteamos una iniciativa para que se ampliara las dotaciones de este ejercicio

para satisfacer todas las solicitudes en el año dos mil quince porque es que la cantidad prevista ha sido insuficiente

que las cantidades se van a pagar que no se preocupen las familias vascas que las cantidades están a pagar se van a pagar se les van a pagar cuándo se les van a pagar esas cantidades señor consejero y qué va a pasar

señor consejero me parece que estemos

que la política social no es una prioridad de este gobierno me podía referir a las ayudas de emergencia social a las que usted no ha hecho tampoco ninguna referencia y es competencia de este gobierno porque este grupo

y cuando un gobierno y el gobierno vasco tiene la competencia absoluta de sufragar las cantidades necesarias para satisfacer las demandas que llegan a su ayuntamiento tiene que hacerlo y este gobierno no lo está haciendo

económica yo le he dado el titular y el resultado de un estudio que concluye que la pobreza intensa crece en euskadi más

hoy cuando lo ha visto imagino que ayer también ya lo pudo comprobar en el citado informe pero no tergiverse la realidad y si tiene que desmentir

con un dato pero no diga que no es así cuando usted aquí no ha proporcionado ningún dato para desmentir esa afirmación

al empleo y la reactivación económica desde luego si este gobierno está haciendo esfuerzos no está haciendo los esfuerzos suficientes a tenor de los resultados

datos que este gobierno no ha desmentido no solo que el ritmo de creación de empleo es menor en euskadi que en el resto de comunidades autónomas señor consejero porque eso es así

es gracias a esas reformas estructurales que un gobierno valiente ha emprendido y no ha sido capaz de emprender este gobierno porque no tienen ni siquiera liderazgo suficiente para

para revertir aquí también la situación y si se ha mejorado las cosas ha sido gracias precisamente a que formamos parte de españa y gracias al impulso de ese espíritu

el crecimiento de la ocupación el último año en el resto de españa es un dato objetivo si usted tiene otro dato para rebatirlo pues tráigalo aquí

y ha sido publicado en numerosas ocasiones a lo largo de los últimos

las últimas semanas concretamente el crecimiento de la ocupación en el resto de españa ha sido el uno coma seis y en euskadi el cero coma tres ese es el dato señor consejero es un dato objetivo que desde luego tiene que llevar a la reflexión a este gobierno y a que vea de una vez por todas que no está haciendo todos los esfuerzos necesarios

como se merece euskadi y es que el comportamiento del mercado laboral en los meses

que el turismo está creciendo en euskadi pero mire es que en españa no hablamos ya de que el empleo haya crecido a un ritmo inferior es que hablamos de que mientras

en euskadi se destruyó empleo y el número

por lo tanto yo creo que ya esas cifras denotan claramente cuál es la realidad en la comunidad autónoma del país vasco resultado de la gestión obviamente y de la inacción en algunas cuestiones absolutas de este gobierno y mire

los ingresos fiscales en concepto y como consecuencia de la recaudación del irpf aumentarían y no lo están haciendo señor consejero

no sé si por cierto usted por eso ha planteado a los ciudadanos subir los impuestos por cierto también para tapar

propias carencias en la gestión del departamento que usted dirige

porque consideramos que el empleo es la mejor política social y es la herramienta fundamental para

en riesgo de exclusión esa es la herramienta fundamental y muchas de nuestras propuestas de resolución van orientadas precisamente a que lanbide de una vez por todas sea un instrumento válido en la búsqueda de un empleo en la intermediación laboral señor consejero es que las cifras son las que son

las políticas activas de empleo es que ustedes donde había una oportunidad no han visto una oportunidad porque no se están con todos los esfuerzos necesarios en ello la mala gestión la cantidad de cobros indebidos nos imaginamos otra institución una diputación foral con esas cantidades en relación a la gestión de otras competencias como puede ser la dependencia señor consejero usted tiene que poner las herramientas necesarias desde luego para que lanbide funcione y para suplir todas las deficiencias en la gestión que estamos conociendo

del pasado viernes pero es que sin una rpt de lanbide lanbide no puede cumplir sus objetivos y los objetivos que tiene previstos de acuerdo a la legislación vigente no sé qué le produce mucha risa pero desde luego creo que no es un tema que sea para reírse

en definitiva señor consejero no creo que tengo un panorama para volver a caer

cae este gobierno y lo hemos evidenciado hoy de forma muy clara

a explicarnos los datos de un informe que nos ha divulgado hoy y que hubiera sido por decoro parlamentario y por respeto a este parlamento mucho más oportuno si usted y este gobierno hubiera querido un debate real en relación a esta situación y

la verdad es que observo con perplejidad confirmada a lo largo de toda la mañana que no esté el gobierno en pleno en un debate

porque si hay algún debate sobre las personas es este pero a la vista está que el eslogan de su gobierno no pasa de ser eso un mero eslogan un gobierno para las personas y también me gustaría decirle señor consejero que

en un pleno pero hubiera estado muy bien que hubiera intervenido usted de entrada y además hubiera hecho una intervención propositiva

sus posiciones más allá de utilizar el turno de réplica y dedicarse a hacer reproches a todos los grupos de la oposición pero sin embargo no desmentir

escudándose en su victimismo para eludir las responsabilidades que tiene como gobierno que es

el deber de afrontar los problemas con prontitud

tampoco he entendido muy bien por qué se ha sentido usted tan herido porque le hemos interpelado porque al final usted es el gobierno y nuestra posición aquí es el de la oposición

es a usted como miembro del gobierno que le toca hoy liderar este pleno y nosotros los socialistas y le voy a reproducir el literal de mi intervención hemos propuesto un nuevo pacto social y le hemos dicho que queremos un pacto que involucre a todos y cada uno de los vascos

un sistema de cohesión social que garantiza los derechos de todos sin exclusiones le hemos dicho también que es lo mejor que hemos sabido hacer desde que tenemos uso de nuestras competencias

debemos contribuir activamente en su defensa y mejora para el futuro de euskadi y que por eso lo que hoy nos estamos hablando aquí nos jugamos el futuro de euskadi

quién ha dicho que todo esté mal desde luego el grupo socialista lo que hemos hecho ha sido un diagnóstico de no conformarnos con lo que tenemos y sí voy a corregir algo de lo que he dicho

dijo literalmente una tendencia buena y tengo aquí entrecomilladas sus declaraciones así que veré si usted confirma o no

hemos venido hablando de pobreza oculta en este pleno y también resulta que hemos terminado hablando de informes ocultos y la verdad es que es

a este debate un informe de esas características sabiendo además con tiempo de sobra que este debate se iba a producir hoy y por lo tanto ese informe podría haberse puesto a disposición de los grupos parlamentarios para que hubiéramos elaborado nuestras propuestas en base a ese informe entre otras cosas que también teníamos encima de la mesa

los parlamentarios de esta cámara pero sobre todo y por encima de todo lo que quiero transmitirle es que me parece que es una falta de respeto más que a los grupos parlamentarios que por supuesto y a este parlamento a los ciudadanos

a quienes hoy dedicamos este pleno por lo tanto creo que esta es una cuestión que se lo deberían de hacer mirar en cualquier caso a lo que debemos llegar es a conclusiones y soluciones y en dos años de gobierno señor consejero no ha hecho ninguna aportación como no sea la última propuesta lanzada

ni con el respaldo parlamentario ni con el respaldo social oportuno desde luego lo que sí supongo que sabrá a estas alturas es que los socialistas

por la sostenibilidad de los sistemas públicos por la educación por una sanidad sostenible y por un sistema social sostenible desde el gobierno

por eso también desde la oposición apoyamos una reforma fiscal que facilitara más recursos a la administración para poder mantener todo el sistema público

mientras interveníamos todos los grupos pero no le he oído nada sobre soluciones que le hemos planteado nosotros los socialistas incluso en este pleno en pnls no le he oído nada de la ampliación de las ayudas de emergencia social a pesar de que existe un mandato de este parlamento

tampoco le he oído nada a usted ni a su gobierno de la necesidad de cumplir con algo que tenemos suscrito que es la creación de un fondo para la cohesión social lo firmaron hace catorce meses y no hay nada a día de hoy

se lo volvemos a repetir hay que mejorar lo que existe hay que actuar de emergencia en lo que no llegamos y hay que poner las bases estratégicas para el futuro

las palabras del secretario general de cáritas en vitoria donde más sentido tiene la reflexión porque es donde más se ha incendiado el debate

ojalá los inspectores fiscales tuvieran el mismo volumen de trabajo hay que mejorar el sistema para impedir que nadie engañe a ningún servicio público por supuesto con ningún euro que los ciudadanos hayan pagado con sus impuestos hay que ser rigurosos

hay que serlo especialmente cuando se trata de gestionar la solidaridad y hay que serlo especialmente cuando se necesitan los recursos más que nunca para los más necesitados y alentamos a nuestras diputaciones a que sean igualmente exigentes

como se es en los controles a los más necesitados no queremos defraudadores en nada ni en la renta de garantía de ingresos ni a la hora de aportar a la sociedad por eso hoy en nuestras propuestas de resolución propondremos mejoras de lanbidey de sus controles y propondremos el compromiso de reforzar contra el fraude fiscal esperemos que todos los que defienden lo primero también defiendan lo segundo eso ya servirá para acercarse un punto al sentido común

hoy aquí queremos defender y proponer políticas posibles dentro de nuestras competencias apostamos por un modelo y social que reparta más equitativamente la riqueza y que sea más solidario con los recursos existentes y esa es una política que tenemos que hacer nuestra

en el debate de las obras sino en el debate de los derechos y tampoco creo que el debate de hoy tenga que ser un debate de reproches si algo nos ha reafirmado en nuestra convicción son los últimos datos conocidos la radiografía que se nos ofreció ayer la que está hoy en todos los periódicos en todas las televisiones y en todas las radios y esa radiografía dice que ni nuestro sistema es tan bueno como unos han venido defendiendo ni nuestro sistema

engañen al sistema y yo creo que tampoco tenemos que perdernos en los datos no podemos perdernos en un campeonato de propuestas tampoco ni podemos perdernos en un debate de reproches los socialistas hemos venido a este debate trabajándolo con quienes hay que hacerlo en la calle con quienes están directamente con las personas que sufren la pobreza no venimos aquí a hacer gala de nada no hemos venido a eso ni podemos sentirnos satisfechos con la realidad

nos sentimos satisfechos de algunas cosas es decir de haber podido impedir que nadie deba elegir entre comer o pagar medicinas que nadie

donde se garantiza el derecho a disponer de una vivienda digna pero con todo esto y con más hay que decir que es insuficiente y que hay que seguir trabajando y no creemos vuelvo a reiterarme que sea bueno que hoy nos encelemos en el reproche no creemos que eso a las miles de personas que necesitan ayuda queremos hablar de actuaciones inmediatas como la ampliación de las ayudas de emergencia social la mediación para que a nadie

hablamos de actuaciones a corto plazo posibles como son los acuerdos sobre condiciones laborales sobre programas inmediatos de empleo sobre reorientación de la formación

debemos empezar a hacer para cambiar esa deriva pensemos en lo estratégico en lo que puede pasar de aquí a cinco diez o quince años eso es en lo que en definitiva podrá ayudarnos a definir la euskadi del futuro la euskadi que queremos construir para nuestros hijos a eso queremos dedicarnos los socialistas vascos en los próximos años
y a eso también hemos venido a este pleno nada más y muchas gracias eskerrik asko

no es para caer en la autocomplacencia pero señor matute estamos algo mejor que el año dos mil trece algo menos mal que el año dos mil trece

que lo avalan los datos son objetivos

que son los únicos que le interesan y cuando reflejan algún dato positivo no le valen porque dice que hay muchas situaciones fuera de las estadísticas un poco más de rigor señor matute

entiendo que no comparta las políticas del gobierno vasco que no son las que ustedes aplicarían pero insisto que están teniendo sus resultados positivos aunque todavía de forma incipiente tampoco veo grandes diferencias con otros ámbitos territoriales donde las responsabilidades de gobierno

erabakiak hartu ditugu eta martxan jarri ditugu bitartean señor garitano se permitió el lujo de decir que no hacía falta ningún plan de reactivación económica aunque ahora

está empezando a hacer algo al respecto en

han concretado sus ciento cincuenta propuestas uno recortes sociales no hay recortes sociales proyecto de presupuesto para el dos mil quince

más de euros para políticas sociales hay un plan de empleo en marcha dando resultados positivos respecto a la fiscalidad

parlamentaria y conocimientos para saber que la competencia es de las juntas generales de los territorios históricos en cuanto a la soberanía estamos de acuerdo

más bienestar solo que hay que gobernar hoy y no podemos esperar a ser independientes para empezar a gobernar y tomar decisiones lehen aukera usted reprochaba antes al consejero que no le había escuchado pues usted tampoco me ha prestado demasiado atención porque yo he dicho

varias de sus propuestas que han mejorado sustancialmente dicho programa y aquí está la carta de la egk que es pública

al gobierno vasco por el cambio de rumbo del programa lehen aukera por lo tanto

estamos de acuerdo con usted cuando hablaba de trabajar todos los días del año en conseguir la creación de empleo y modificar siempre para mejorar el sistema de protección social que tenemos señor maneiro y aunque a usted le moleste claro que le voy a repetir que en euskadi estamos mejor

y por encima de la media europea parece que le molesta que estemos mejor en euskadi porque lo entiende como desigualdad y privilegio dice que nosotros estamos obsesionados con españa señor maneiro

el único obsesionado con españa es usted es para estar orgullosos del acuerdo alcanzado hace ahora veinticinco años que ha permitido una sociedad

no podemos caer insisto en la autocomplacencia ni lo pensamos hacer hemos de seguir trabajando juntos para que no haya una sola persona en euskadi en situación de desempleo pero no es cierto que estamos peor que hace un año el desempleo ha descendido en los dos últimos trimestres del año dos mil catorce y hoy existen cerca de ocho mil personas menos en desempleo que no es suficiente

pero reconozcamos que se está trabajando y que el esfuerzo también económico está empezando a dar sus frutos lo importante es el cambio de tendencia que ha permitido por primera vez

usted pide que el gobierno dé cuenta de los resultados obtenidos por las medidas puestas en marcha y es su obligación de oposición requerir dicha información

del grupo que sostiene al gobierno he dado cuenta de muchas de esas medidas también creo

hubiera solicitado la comparecencia del consejero en comisión pero claro entre que usted es el único representante de upyd

en la prensa que a usted tanto le gusta pues así nos ahorramos de esta forma ir a la comisión y aquí

partido popular en su primera intervención hablaba de los datos del informe de pobreza y desigualdad de dos mil doce a los que no me voy a referir

tendremos ocasión de tratarlos más sosegadamente cuando dispongamos del mismo que yo

y los podamos analizar detalladamente no le quepa la menor duda señora garrido que la prioridad del gobierno vasco es la reactivación económica y la creación de empleo

empezando a dar la vuelta a la tasa de desempleo en euskadi habiéndose generado empleo neto este año dos mil catorce a pesar de que desde el principio de legislatura

que tanto dos mil trece como dos mil catorce iban a ser años muy duros

mucho camino si se quiere pero se han tomado medidas cuyos resultados avalan de forma incipiente que han sido correctas y eficaces dichas medidas

ya que empezamos a ver los primeros datos que nos permiten mirar el futuro con cierto positivismo compartimos con usted señora garrido

es la intermediación laboral ya me hubiera gustado que lo hubiera tenido tan claro cuando se puso en marcha en la legislatura pasada y ustedes ayudaron al gobierno socialista a ponerlo en marcha porque las prisas no son buenas consejeras y ya sabemos cómo se puso en marcha lanbide y la verdad no sé cómo se atreve poner a españa de ejemplo de nada de nada

por no hablar ya de la corrupción no vale de ejemplo para nada en cuanto al partido socialista

ya tuvimos un debate monográfico al respecto y además estamos trabajando en la ponencia sobre la ley de vivienda que trajo el partido socialista el proyecto de ley de vivienda

nos remitiremos a los debates de la misma no compartimos la sectorización de la pobreza a la que ha hecho referencia tanto la señora mendia como el resto de portavoces hablaba de pobreza de mujeres de pobreza de inmigrantes de pobreza energética de la infancia nosotros creemos que

en sentido amplio y darle un tratamiento de conjunto sin parcelarla por sectores insisto mencionaba también la señora mendia el pleno de política general y la verdad que me ha dado la sensación más de una vez a lo largo de la mañana de que estábamos ante un pleno de política general habida cuenta de la cantidad de temas que hemos tratado ser solidarios nos ha permitido crecer a todos y todas a la sociedad vasca en general decía

es imprescindible mantener y mejorar en lo posible el sistema de protección social que tenemos la protección social no es gasto es inversión decía

estoy utilizando sus palabras estamos de acuerdo también y le voy a poner un ejemplo ilustrativo ahora

los datos son meridianamente claros perceptores y perceptoras extranjeros de rgi asciende

personas y cotizan a la seguridad social cuarenta y nueve mil personas extranjeras por lo tanto veintitrés mil perceptores inmigrantes extranjeros

cotizando a la seguridad social datos objetivos

también en este parlamento el gobierno no ha eludido en ningún momento sus obligaciones ha puesto en marcha el plan de empleo y el de la reactivación económica

sus frutos por lo tanto señora mendia no es cierto que este gobierno no ha hecho nada usted lo sabe y así lo demuestran los datos que son tozudos

trabajemos conjuntamente para continuar por la senda del crecimiento y para ello necesitamos la colaboración de todos y todas besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

las propuestas y a las cuatro volvemos a iniciar el debate para negociar tienen que negociar

lauetan lehenago lauetan dos y cuarto para meter las respuestas en el registro cuatro para empezar y si se necesita mas tiempo